las iniciativas de mejoras señorías que pueda impulsar una administración educativa pierden gran parte de su eficacia

si no forman parte de un plan de mejora general que les confiera una perspectiva común

hacia unos objetivos explícitos y evaluables por eso se cometen errores como el de hamaika esku que no podemos

con un objetivo estratégico común que levante las expectativas que marque un horizonte y hacia el cual se supediten todos los servicios de la administración

y puedo decirle señoría que el instrumento y la herramienta que hoy pertenece al sistema educativo vasco nos supuso un importante avance

y a la hora de calibrar mejor todas las iniciativas que debíamos impulsar para establecer las prioridades más adecuadas para la consecución de los objetivos fijados

evaluar el progreso de los centros siempre teniendo en cuenta que la administración sus servicios debieran estar siempre al servicio valga la redundancia

y nos fue muy útil y por eso planteo esta proposición no de ley para que el departamento de educación se dote también de ese elemento básico de organización y coordinación de todas las iniciativas de mejora de los resultados escolares

inconexas no sirven no valen hay que ordenar alinearlo y establecer ese objetivo estratégico que nosotros lo establecimos en un cinco por ciento de mejora para que los centros sepan hacia qué horizonte caminar es necesario en consecuencia establecer un objetivo estratégico general que actúe como horizonte motivador

que señale ese objetivo estratégico general a toda la comunidad educativa el camino para la mejora y que le estimule en su que hacer educativo diario parece

es sencillo de decir es complejo de hacer y es muy importante y tenemos este buen sistema educativo porque hemos tenido el sentido común como comunidad de ir construyendo unos detrás de otros sin destruir nada de lo valioso por eso tenemos un buen sistema es necesario determinar los ámbitos de actuación del plan en primer lugar y con carácter prioritario los centros educativos que son sin duda la célula básica de todo el sistema así se debe continuar trabajando sobre la base de ese extraordinario circulo virtuoso

primero más análisis de resultados más elaboración y puesta en práctica de un plan de mejora de cada centro cuyos frutos podrán ser recogidos en la próxima evaluación diagnóstica es una forma de trabajar que los centros conocen ya valoran positivamente

y participan y se comprometen imbricándose de forma estrecha en la evaluación y en la mejora

se evalúa para conocer y mejorar pero también hay que trabajar en todos los demás ámbitos en el ámbito del sistema y la administración educativa y sobre todo en los servicios y programas de la viceconsejería de educación en el plan de formación del profesorado que es una herramienta imprescindible

en consecuencia es necesario marcar una serie de objetivos específicos para cada uno de estos tres ámbitos de actuación y finalmente es necesario establecer

cómo se ha progresado qué es lo que hay que fortalecer así se puede avanzar hacia ese objetivo estratégico general que debe ser cuantificado cuantificable y objetivable

si nos acercamos o nos alejamos del objetivo como les digo parece evidente pero no es sencillo no es sencillo hacerlo pero solo

solo el trabajo ordenado planificado y evaluado es el que produce mejoras no vale por tanto no valen las panoplias de actividades parciales e inconexas no valen

el plan debe ser general explícito público proyectable pues no solo atañe a la administración educativa

porque cuando las familias participan saben lo que quiere hacer la administración educativa la educación progresa significativamente exponencialmente y esa es señorías nuestra propuesta una propuesta sencilla y una propuesta en la que tengo que decir que he encontrado

que se muestran receptivos para respaldarlo y que efectivamente he de decir que si bien la propuesta que nos hacía de enmienda el gobierno iba por otros derroteros finalmente yo creo que ha comprendido que este debe ser el eje

avanzo ya mi agradecimiento a todos los grupos de la cámara por su comprensión y por que además una propuesta de esta naturaleza va a ayudar notablemente
a mejorar la educación vasca nada más y muchas gracias eskerrik asko

efectivamente porque tenemos un acuerdo en este punto en una propuesta del grupo socialista sobre la necesidad de un plan de mejora

que todos los grupos de esta cámara al menos la mayoría asumamos que nuestro sistema educativo debe mejorar sus resultados

y retos que afrontar creo que es ya un paso muy importante y además lo hacemos a la vista en este caso evaluaciones realizadas internas y externas y a la vez porque hemos conocido los datos arrojados por el último

confirma esas carencias de la educación vasca especialmente en términos de excelencia educativa nosotros tenemos no que compararnos con la media española ni tenemos que compararnos con la media de la ocde nuestra comunidad es una comunidad rica

comunidades europeas desde las regiones europeas que más dinero más recursos públicos dedica a la educación más gasto por alumno tiene las comunidades que más esfuerzo hacen por la educación y por eso nosotros tenemos que tratar de estar en los niveles de cabeza en resultados

nuestro entorno y de la unión europea y no lo estamos estamos muy por detrás

especialmente muy por detrás en lo que se refiere a datos de excelencia los datos

esa necesidad la responsabilidad aquí de la administración pública es hacerlo manteniendo como se ha dicho también antes los objetivos compartidos por todos de calidad y de equidad de nuestro sistema se trata de poner en marcha medidas que conjuguen calidad con equidad son las dos claves sobre las que tenemos que trabajar se trata

las medidas necesarias las medidas precisas las que son en este momento adecuadas para mejorar si se responde a un programa de acción concreto explícito con unos objetivos claros o se están poniendo parches o a través de medidas aisladas

lo que estamos tratando es quizá poner un nombre a lo que ya se viene haciendo eso es lo que denunciaba el otro día un grupo en comisión y nosotros creemos que hoy con el acuerdo al que lleguemos los grupos hoy pues yo creo que

de poner en marcha un plan un plan concreto un plan que podamos compartir y que podamos analizar aquí en esta cámara en el fondo yo creo que eso es lo que pretende la iniciativa socialista pretende que nos preguntemos nos lo hemos

hamaika esku que nosotros consideramos que apunta medidas en la buena dirección y que puede suponer desde luego un apoyo y un refuerzo necesario

para muchos centros que en este momento lo necesitan pero si ese programa de hamaika esku además de caminar en la buena dirección es insuficiente no resulta novedoso o al menos

de los cincuenta centros que más necesidades en este momento reclaman sino poder habilitar poner en marcha un plan de medidas que pueda ser útil para la generalidad del sistema yo creo que

eso es lo que pretende esta iniciativa con este acuerdo yo desde luego me quedo con eso con el que nosotros hoy a través de este acuerdo comprometemos también

al grupo que apoya al gobierno y en ese sentido ese compromiso por el que instamos

primero a seguir continuando con ese programa de mejora de la calidad del sistema educativo segundo que se preste una atención

especial atención a los resultados de esas evaluaciones internas y externas

con la equidad los factores sociales económicos y culturales que inciden en esos resultados que se implementen aquello que funciona lo hemos visto en comisión es preciso extender aquello que funciona bien es preciso también tomar nota

resultados aportan para a partir de ahí poder extender esas prácticas metodologías etcétera al conjunto de los centros elaborar

un plan y presentarlo ante la comisión antes de finalizar el año yo creo que eso es muy importante creo que va a complementar muy bien lo que en comisión la consejera presentó como el plan de medidas hamaika esku yo creo que un plan de estas características puede ser efectivamente necesario en este momento más allá de

demanda de esos cincuenta y cuatro centros y además un compromiso para que este plan incluya de manera específica la formación del profesorado

de ver si con este acuerdo hoy comprometemos al departamento efectivamente a ponerse

en un plan que podremos seguramente discutir y discrepar en algunos aspectos pero que podemos tratar en comisión para en este caso
remar todos en la misma dirección para que nuestro sistema educativo pueda alcanzar mejores resultados en los próximos años nada más y muchas gracias eskerrik asko

lehenengo eta behin continuar con el proceso de mejora de la calidad del sistema educativo vasco

así como a los factores sociales económicos y culturales que inciden en dichos resultados horixe bera jasotzen du erdibidekoaren lehenengo puntuak guk continuar

elaborar y presentar ante la comisión de educación un plan de mejora de los resultados escolares antes de finalizar un año esan dudan moduan aurkeztuko da

ekarri duela inacción y desacuerdo

cuando se consiguió un amplio acuerdo inakzioa

erantzunen txandara pasatuz celaá andrea zurea da hitza bueno para de nuevo agradecer el apoyo

y decirle que no es un corta y pega si se hace verdad

ciertamente nos trae un plan de mejora el plan de mejora tiene que integrar las medidas y las medidas son medidas con recursos es decir el plan de mejora no es nuevo no es una novedad se presentó en el dos mil diez yo lo presenté y tenía un tiempo

procede su evaluación y procede su implementación

es evaluación diagnóstica es plan de mejora de cada centro es refuerzo del liderazgo de los equipos directivos y es poner toda la administración educativa y los servicios

para ayudar a que los centros mejoren si en realidad tuviera que hacer algo con la educación vasca en primera responsabilidad me fijaría sobre todo en la mejora de los centros educativos

el centro educativo su diversidad y ver cómo mejorar el centro educativo desde el centro educativo eso recoge todo señor agirrezabala recoge todos los recursos que sean menester lo que no recoge

eso no recoge porque para que eso se justifique es preciso previamente elaborar un plan que efectivamente alinee

y es verdad el gobierno en principio con respecto a esta propuesta contestó con hamaika esku que sabe que al menos dos grupos

no solo por estigmatizar en un ranking de abajo arriba que no de arriba abajo a cincuenta y cuatro centros o cincuenta y tres centros de esta comunidad

por distintas características no solo por eso si no porque eso sí que es una improvisación nos lo presenta

y esto hace referencia a muchos centros de primaria y por arte de birlibirloque se nos plantean una serie de medidas ya conocidas

hamaika esku y es verdad el gobierno lo modifica y retira el hamaika esku de esta propuesta de

enmienda que nos había hecho y se apunta al plan de mejora y afirma tener la intención de continuar mejorando la calidad

es decir si empezamos a construir en positivo yo creo que vamos a lograr muchos mejores resultados es verdad

y es cierto como usted dice que hamaika esku para su grupo y para el mío resultó

y negativa y negativa no esperábamos eso no esperábamos eso pero bueno yo creo que un plan de mejora

no de ninguna manera descarta los recursos todo lo contrario es tratar de alinear de poner todos los servicios de la administración educativa

en función de lo que significa los planes de mejora de los centros porque hay esta el quid de la cuestión para llegar a la excelencia en coger la diversidad asumir esa diversidad

de ahí la mejora yo creo que el gobierno por su propia naturaleza ha de tener buena voluntad lo que pasa es que a veces necesita alguna instrucción y esta es una con toda humildad lo digo el plan de mejora es fundamental por qué

las medidas que se vayan a ir adoptando sean coherentes estén al servicio y esto es fundamental lo así espasmódico en educación no va es que no va no va la coyuntura no va y tenemos que contar con el tiempo porque se necesita tiempo

y tenemos que conseguir excelencia pero ojo sin perder ni un gramo de equidad nada más y muchas gracias

señora presidenta y desde el escaño para decir simplemente que creemos que está es una manera de avanzar

el que tomo esta cámara sobre este mismo asunto que efectivamente hay que hacer análisis que tenemos que hacer evaluación que hay que que

que no se trata solo de recursos que esta comunidad es la que más recursos dedica a la educación que no solo

funcionar mejor organizar mejor los centros y necesitamos

a los centros que peores datos están aportando a aquellas cosas que funcionan bien porque por supuesto que hay que atender a la diversidad

hay muchos centros en nuestra comunidad que teniendo el mismo nivel de inmigración o de alumnos con familias en situaciones económicas socioeconómicas muy complicadas están aportando

luego no se trata solo de hacer un planteamiento de que los centros que tienen inmigración son los que van mal y hace falta simplemente dinero y profesores de refuerzo sino que hay que simplemente funcionar de distinta manera eso es lo que se trata con un plan con un plan que analice la situación que nos diga qué es lo que está funcionando bien en los centros con similares características y que eso lo podamos aplicar al conjunto general del sistema para elevar los resultados de todos que se trata

que en este momento mas lo necesitan pero que podamos elevar

el nivel y los resultados de los alumnos en el conjunto general del sistema educativo

señora celaá y es un programa que se presenta dando cumplimiento al programa de gobierno y en esa línea seguirá aunque no fueran proyectos que estuvieran previstos cuando a usted le tocaba este menester

de servicios que de ninguna manera se han ofertado al azar y que en su momento en la comisión se explicó largo y tendido cuál había sido el criterio para definir

tokitik zure baimenarekin señora celaá es que

a hacer su propio camino los planes de mejora y con indicadores de evaluación clarísimos

por lo tanto en el discurso lo que se ha dicho aquí

lo he dicho en mi primera intervención nosotros no vamos a dificultar que se apruebe

el acuerdo que han conseguido entre ustedes por lo tanto en lo que se refiere al discurso de que

el núcleo de los centros totalmente de acuerdo lo que yo he dicho

ha sido que hay un elemento que no se ha incorporado sobre todo que hay dos cuestiones que nos llaman la atención primero un elemento que no se ha incorporado

los recursos señor oyarzabal que no es solamente dinero cuando estamos hablando de recursos estamos hablando de personal estamos hablando de ratios estamos hablando de asesoramiento de los centros es decir no solamente de dinero estamos hablando de recursos

los cuales tenemos que adecuarlos a los objetivos y a las necesidades que tiene este sistema educativo vasco por lo tanto no me vale

que hay más cosas que dinero si yo estoy de acuerdo con usted que también habrá que evaluar habrá que revisar

pero también hay que revisar los ratios hay que revisar con respecto a las necesidades de profesores y profesoras en los centros

eta bukatze aldera ese es uno de los elementos que echábamos en falta y el segundo elemento

gracias señora presidenta buenas tardes a todos la verdad es que

no me voy a extender demasiado porque los puntos que vamos a tratar aquí han sido ya debatidos y tratados en otras ocasiones en esta cámara

en la proposición la transparencia el acceso a la información el control de las contrataciones y en general

deben ser los ejes fundamentales de la acción política la transparencia es un principio de buen gobierno como digo cada vez

debe ser lo más amplia posible y por tanto ese objetivo de administración transparente debe ser perseguido y conseguido en todo el ámbito de la administración y por tanto también en el conjunto de sociedades y organismos públicos que dependen de dicha administración

porque creo que así se medirá seguro y saldrá en este debate que existe un anteproyecto de ley de administración pública del país vasco en el que se establece una serie

en uno de sus apartados que tanto la organización administrativa como las competencias la normativa los órganos de gobierno personal directivo puestos de trabajo funciones y sueldos personas liberadas planes y programas evaluación de dichos programas y presupuestos cuentas anuales endeudamiento así como informes

publicadas y esto esto que será de la administración pública vasca por ende y por tanto va a ser también aplicada a e i te be eso lo tenemos claro pero creemos que existe un punto que quizás no aparezca con tanta claridad en ese anteproyecto

pública vasca que es lo referido a la contratación y una administración y por extensión las sociedades que de ellas dependen que quiera conseguir transparencia plena

sea lo más diáfano posible que los contratos públicos todos

que conozcamos es cierto que con límites pero que conozcamos con quién se contrata por cuánto se contrata cómo se contrata y qué normas siguen esa contratación y creemos que a pesar de que es verdad que e i te be tiene transparencia tiene ya ganada una transparencia

tenemos un precedente en la legislación española un precedente en esta materia que tiene que ver con la televisión autonómica catalana

sometido a debate en la cámara catalana el proyecto de ley como decía para la transparencia y sostenibilidad del sector de la comunicación es verdad que este proyecto es muy criticable en muchísimos aspectos porque aunque

lo decía y utilizaba una palabra tal como desgubernalizar la corporación catalana de medios audiovisuales y del consejo audiovisual de cataluña aunque como digo eso no era más que en el título porque luego lo que venía es a intentar utilizar la televisión catalana con fines absolutamente partidistas

algunos aspectos positivos y uno de esos aspectos positivos

es que decidía de una forma clara poner fin a la opacidad y el posible oscurantismo buscando una mayor transparencia sobre todo en lo relativo a un punto en el que aquí tenemos mucho que ganar en esta comunidad que es

allí decía entre los medios públicos catalanes de la corporación catalana de medios audiovisuales

en esa ley en aras a una mayor transparencia se introducían modificaciones a las normas y así se establecía que quedaba prohibida la inclusión de cláusulas de confidencialidad u otras medidas tendentes a reducir o eliminar la publicidad contractual de los contratos suscritos por la corporación

para facilitar la competitividad y la puesta en valor del sector audiovisual en su conjunto consagrando el carácter público

de todos los contratos en nuestra comunidad autónoma y en e i te be y con relación

como decía al margen de otros aspectos en el que también tenemos que ganar en transparencia pero con relación a la contratación con la excusa de la confidencialidad y en esta cámara ya ha salido ese debate

firmas de contratos de los que no se da la cumplida cuenta y eso lo miremos por donde lo miremos es contrario a una elemental transparencia por ello existen parcelas como la de la contratación de los programas externos al margen

así no se aplica las mismas normas en contratación de productos de medios productivos que los que se hacen para la prestación de servicios o adquisición de productos para estos para los de prestación de servicios o adquisición de productos se aplican en todo caso las garantías de plazos de publicidad

y la excusa es la especificidad de la contratación de la programación y que esa contratación de productos audiovisuales o que el dar la información de esa contratación de productos

o que incluso puede ir contrario a la confidencialidad y se pone de manifiesto

sin embargo estamos viendo como he dicho aquí que otras administraciones están haciendo frente a este aspecto

a todos los aspectos de la administración incluida la contratación en todos sus ámbitos en ellos también se alcance la claridad y la transparencia necesaria parece que experiencias de la comunidad autónoma catalana que otras son admiradas mucho sin embargo aquí parece que no son

y por ello queremos decir desde este grupo que si queremos recuperar espacios de confianza con la ciudadanía y de incrementar nuestros niveles de credibilidad desde los poderes públicos debemos dar muestras fehacientes de nuestra apuesta por una verdadera transparencia y como digo debemos hacerlo en todos los ámbitos

va a hacer extensiva a e i te be pero también en otros en los que podemos

como he dicho al principio de mi intervención este debate no es nuevo se ha tenido en esta cámara en otras ocasiones y este asunto fue contestado por la consejera en la comisión de control de e i te be

que la administración vasca promoviese una regulación específica al respecto para garantizar la transparencia en lo relativo a la contratación de programas audiovisuales aunque también dijo que ello dificultaría la operatividad funcional de e i te be y podría ser podríamos estar de acuerdo

pero en cualquier caso creemos que entre transparencia y operatividad se debe dar se debe primar la transparencia que la prioridad la debe tener la transparencia

creemos que dentro de la gestión que viene realizando e i te be existe todavía margen de mejora en estos aspectos y que a través de esta propuesta lo que pretendíamos es tener más herramientas esas herramientas que se dijo aquí que podíamos dotarnos de ella que nos permitiesen a todos tener un mayor control de e i te be en todos los aspectos en la contratación también porque estamos hablando de la televisión de todos pagado con dinero

de claridad y de transparencia por ello hemos firmado finalmente una transacción

porque no se trata de traer una ley más sino que se trata de garantizar la transparencia tal vez

la ley cinco barra ochenta y ocho introduciendo un apartado específico relativo a la transparencia a la claridad y a la optimización en la gestión de e i te be por eso hemos firmado esta enmienda con upyd para ello le pedimos el apoyo a todos los grupos porque si de verdad

que este debe ser un bien irrenunciable en la gestión pública es hora de pasar

sí gracias presidenta de manera muy breve para decir que básicamente estábamos de acuerdo

planteados en la proposición no de ley del partido popular es cierto que hay que mejorar la transparencia en todos los niveles de la red pública y de ella forman parte sin duda todas las empresas y organismos adscritos o participados por la administración como es la radiotelevisión pública

por las connotaciones que tiene de poder en la sociedad y en la transmisión de mensajes a los ciudadanos y por lo tanto de manipulación también de los mismos si es utilizada al servicio del poder de determinados partidos políticos o de determinadas ideologías o si se permite que sea controlada por grupos de presión

llanos en fin que haya una mayor transparencia que haya un fácil acceso a la información

que los contratos públicos se sometan a las normas de la transparencia

en los contratos para lograr estos objetivos el grupo popular planteaba presentar que el gobierno presentara un proyecto de ley de transparencia para e i te be nosotros estamos de acuerdo con estos objetivos

estábamos en desacuerdo con la propuesta o con la solución que proponía el grupo popular para alcanzar esos objetivos nosotros nos preguntábamos no sería más lógico que se hiciera una modificación de la ley de creación de e i te be

en ella los aspectos relacionados con la transparencia o tal como dice finalmente la transaccional que hemos firmado para introducir un apartado específico sobre transparencia

a la que llegamos es que sí que nos parece que es mejor la opción

por la enmienda de upyd y a la señora llanos ahora también le parece mejor esa fórmula y por eso hemos llegado a esa

para e i te be también habría que hacer leyes específicas de transparencia para todas las empresas públicas y organismos autónomos que dependen del gobierno vasco a nosotros nos parece más normal más proporcionado más lógico más razonable

y vayan lógicamente en una ley específica en una ley de transparencia específica como en su momento propusimos aplicable a toda la administración general y a todos los organismos de ella dependientes finalmente el gobierno vasco lo que va a hacer es aprobar una ley de

una ley de transparencia o un apartado referido exclusivamente a la transparencia pero en todo caso una normativa

y en el caso de e i te be ya que tiene una ley específica lo que proponíamos es introducir en esa ley un apartado concreto o artículos

en los que se haga referencia a los asuntos relacionados con la transparencia y por eso proponíamos la enmienda que registramos que es la de incluir

ya existente pero no crear una nueva ley de transparencia solo para e i te be en fin esta era nuestra propuesta al grupo popular le parece razonable y por eso nosotros hemos firmado esa transaccional gracias

arratsalde on guztioi los socialistas

hemos demostrado que apostamos claramente por la transparencia en todas las actuaciones de la administración y de lo público

incorporó una serie de medidas como el portal irekia la iniciativa del gobierno abierto y otras que hicieron que nuestra comunidad autónoma escalara

hasta el segundo en el ranking de la transparencia entre las comunidades autónomas del estado español en la pasada legislatura se abrió un camino no exento de críticas incluso

que el actual gobierno sigue transitando o al menos estas son las intenciones manifestadas en esta legislatura nos ha tocado desde la oposición liderar las iniciativas sobre transparencia y sobre todo hemos incidido en el asunto de e i te be que hemos sido los que más hincapié hemos hecho en que en el ente e i te be se recojan elementos que permitan esa transparencia

propusimos hace unos meses el control de las contrataciones con productores audiovisuales

llanos como algo que no entraba en el contexto global nosotros lo propusimos y lo conseguimos hacer es decir el control de la actividad económica y asimilar

con empresas audiovisuales de e i te be con el sistema de la administración

eso lo incorporamos al boletín oficial de este parlamento de noviembre del año pasado por lo tanto creo que desde esa iniciativa pasando por otras como la que hace mes y medio partiendo iniciativa nuestra en la misma comisión de control de e i te be aprobó una enmienda de transacción en la que se insta a la dirección general de e i te be a que a través de su pagina web

añadiendo que en el proyecto de ley de administración publica que el gobierno se ha comprometido a través de esta cámara esa disposición se amplié

por lo tanto creo que queda suficientemente

como en el conjunto del sistema público vasco y dicho esto me gustaría comentar algunos aspectos de la iniciativa que nos trae hoy aquí el grupo popular y de las enmiendas que se le han planteado como ya he comentado

abordarse en el sentido más amplio con carácter general para que afecte a todo el sistema publico y qué mejor oportunidad para lograrlo que un proyecto de ley que se supone está en camino hacía este parlamento por supuesto que en nuestro grupo vamos a estar alertas sobre el cumplimiento del calendario legislativo aunque esté parece que marcha a un ritmo

pero sobre todo lo que vamos a controlar es el contenido del proyecto de ley de administración publica vasca para comprobar de manera fehaciente si les incluyen las promesas que anunció

sobre la transparencia estén ustedes seguros señorías de que seremos rigurosos en este aspecto y que de no reflejarse de manera concreta y precisa enmendaremos de forma que todos los grupos de esta cámara podamos pronunciarnos al respecto de la transferencia en esa prometida ley de administración publica vasca desde nuestro punto de vista

tanto en e i te be como en todo el sistema público vasco no estamos por lo tanto de acuerdo con una legislación ad hoc la transparencia debe ser algo transversal

especializarlo en diferentes ámbitos desde nuestro punto de vista

es desenfocar el asunto de la transparencia esta iniciativa ha permitido entre otras cosas

de eludir el debate de cara sobre este asunto porque no tienen precisamente el grupo eh bildu un comportamiento ejemplar

en el grupo e i te be por ejemplo

en esta cámara que el control efectivo inmediato de las convocatorias de plazas para las bolsas de trabajo

controlado por el comité y por el consejo de administración han pactado con el grupo que apoya al gobierno una normativa elaboración de una normativa que

sobre la cual llevamos tres meses y no sabemos absolutamente nada es la misma actitud

parecido mantuvieron cuando nosotros propusimos iniciar de manera inmediata

y eh bildu pactó con el pnv dar una respuesta en el plazo de dos meses y han pasado ya once y que yo sepa no se ha hecho nada eficaz en este sentido lo mismo que cuando en el consejo de administración los consejeros nombrados por este parlamento a propuesta del grupo eh bildu avalan una convocatoria de empleo público en la que lo único que está claro es que se va a destruir empleo todo lo demás es oscuro y no está absolutamente nada claro ahí no hay nada ninguna transparencia en esa convocatoria de empleo público desde nuestro punto de vista igual que cuando estos mismos consejeros

que se hace por parte del grupo socialista sobre la previsión de determinados gastos aludiendo que no se debe politizar el consejo de administración de e i te be o que la

de información de lo que va a costar el despliegue respecto a cierto evento es considerada

sean precisamente un ejemplo de apostar por la transferencia señor maneiro efectivamente nos trajo una enmienda de transacción pero que

con el grupo popular efectivamente sobre la base de la enmienda de totalidad propuesta por upyd en la que se dice que se modifique la ley

del ente público radio televisión pública vasca nosotros creemos que puede ser pertinente

pero no precisamente hacerlo exclusivamente para que

en e i te be nosotros apostamos por la transparencia en todos los ámbitos también en el ámbito de e i te be queremos que se profundice en nuestra comunidad en la transparencia de lo público

es analizar con detalle y rigor el proyecto que nos remita el gobierno asegurar que cuando llegue esa ley al boletín oficial contenga todos los elementos de control

desde nuestro punto de vista esta es la formula más rápida y más eficaz para conseguir que la transparencia aparezca en el boletín oficial del país vasco creemos que eso

hablan de volver a que el gobierno empiece con un proyecto de ley de modificación lo cual nos llevaría

como he dicho antes precisamente no se está este gobierno simplificando o no se está manifestando demasiado rápido en la traída a este parlamento de sus proyectos de ley por lo tanto insisto la manera más rápida más eficaz de que la transparencia llegue a todos los ámbitos de lo público y también al ente público e i te be es que analicemos ese proyecto de ley que analicemos el proyecto de ley de administración pública vasca que en ese ámbito se recojan

estaremos apostando realmente por la transparencia el resto

no queremos hacer una crítica rotunda de las intenciones

que han inducido al proponente al grupo proponente al partido popular como a los enmendantes en que quieren la transparencia pero nosotros creemos

que hay que ir por lo rápido que hay que ir por la vía

que tengamos la transparencia incorporada a todo el sistema público vasco muchas gracias eskerrik asko

organización empresarial planificación corporativa normativa de aplicación documentación profesional resultados

informazio badago información general de proveedores documentos de interés

preguntas frecuentes perfil del contratante instrucciones eta abar eta abar eta

gracias de nuevo señora presidenta yo creo que aquí

y yo creo que un poco por parte de casi todos los portavoces salvo el portavoz de upyd

o que todo va a venir de la ley de administración yo puedo estar de acuerdo en que se puede plantear la modificación de la ley de e i te be puedo estar de acuerdo pero precisamente por lo que ha salido aquí porque es la televisión de todo y claro que se pueden plantear cosas pero no se trata de hacer un favor a e i te be yo formo parte

quiero que e i te be vaya bien pero también quiero que sea una televisión plural

porque está pagada con el dinero de todos cómo garantizar eso es a través de la ley pero probablemente para llegar a esa ley el debate sería amplio y de tiempo y sin embargo el planteamiento de introducir un punto en el que yo creo que todos los grupos

podemos estar de acuerdo que es introducir esas normas de transparencia pues podría ser más rápido y más fácil de llegar a ese acuerdo sin cerrarnos a que haya un debate posterior yo al señor maneiro le tengo que decir que no me importa decir que

hemos llegado o se acerca más a una enmienda de upyd yo no tengo especial celo por la paternidad de las iniciativas yo lo que

que no nos van a votar a favor pero cómo sea o el medio si es más upyd menos pp pues tampoco es de excesiva importancia por lo menos

portavoz que hoy está aquí yo al partido socialista le tengo que decir que es verdad que hay una ley una ley que es verdad que está tardando en venir

uno de los aspectos en los que se establece de excepciones a ese derecho de acceso precisamente está la confidencialidad de los datos de carácter comercial e industrial el secreto profesional y la propiedad intelectual industrial la garantía de confidencialidad o el secreto

en toda la administración en su conjunto se aplicarían de forma diferente así se hiciese una normativa específica para e i te be y con relación al aspecto concreto al que se trajo aquí a debate

de la contratación de los productos creo que si se establece una regulación específica

que a lo mejor estableciendo o introduciendo una normativa específica eso se podía pero que estaría la operatividad en todo caso

y es evidente yo también puedo estar de acuerdo con usted señor etxebarria que hay que intentar que esa operatividad y que esa buena gestión de e i te be no se vea mermada por determinadas normas pero también estará conmigo en que hay que llegar a una ponderación entre esa transparencia y esa operatividad

todos demandamos transparencia no podemos luego buscar excusas a esa transparencia

proyecto de ley catalán que tiene muchas cosas que nosotros no compartimos y de hecho presentamos una enmienda a la totalidad este grupo en la cámara catalana

lo matizaba mucho más que aquí mucho más que aquí entonces yo lo que creo es que

podríamos llegar a ese aspecto y antes de referirme un poco más a lo que ha dicho usted

usted tiene un concepto de la rapidez y la eficacia el grupo socialista que este grupo discrepa un poco y usted ha hablado de la ope

la ope fue al consejo de administración no de este mes el anterior y ustedes se abstuvieron y la forma más rápida y más eficaz de que esa ope no tuviera lugar

y no se abstuvieron y ahora trae aquí una iniciativa para hacer una cosa que ustedes no hicieron en el consejo de administración pues ya le digo la rapidez y la eficacia la entendemos de forma diferente

haberlo hecho allí y es más rápido y más eficaz introducir unas normas de transparencia a través de la modificación de la ley del ente que no esperar a la ley de administración pública y no se preocupe que de la ope tendremos más me va a contestar ahora pero yo le volveré a contestar la semana que viene que vamos a debatir sobre el tema y yo

y aquí esto es una fotocopia del pantallazo en el que se establecen todas las normas yo ya le he dicho que hay cosas en la que estamos avanzando y que hay cosas en las que

pero también hay cosas en las que mejorar en la transparencia

y de forma mucho más eficaz si esa evidentemente siguiendo la línea de los principios contenidos en ese anteproyecto de ley de administración vasca pero introducimos un apartado en esa ley que regula actualmente el ente que tampoco quita para que en un futuro desde el consenso como usted bien dice porque es la televisión de todos pagada con dinero de todos se puedan llevar a cabo modificaciones que mejoren la gestión y la andadura de nuestra televisión
y de nuestra radio nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

o sea aquí no es una cuestión de todo o nada es una cuestión de todo nosotros creemos

por eso nosotros apostamos por la ley de administración pública vasca que en la ley de administración pública vasca se recoja

usted ha sacado un proyecto nosotros he dicho en mi primera intervención analizaremos y enmendaremos para que en esa ley de administración pública vasca se recojan todos aquellos aspectos

sea transparente en el tema de los contratos efectivamente pero es que usted sabe que cuando

que aprobamos asimila los contratos de e i te be o sea el procedimiento para contratar en e i te be con la administración léase el boletín lo tengo ahí arriba no me lo he bajado pero léaselo

es así los contratos dijimos que se asimilaban con la administración y en cualquier caso va a haber una ley de administración pública vasca los plazos dice usted pues por supuesto que es más fácil hacer esto

que instar al gobierno a que elabore un nuevo proyecto de ley o que modifique una ley que ya está en vigor claro que es mucho más fácil cuánto le damos

instando al gobierno a que haga ese anteproyecto lo traiga a la cámara año y medio

con la votación del otro día del consejo de administración sobre la convocatoria pública de empleo

que pudo ser más rotunda su oposición porque dijo que no no sé la nuestra fue clara fue de no aceptarlo y usted y yo sabemos

ustedes y nosotros hubiera salido igual igual es decir en el tiempo lo mismo patatas el día

con la mayoría suficiente aprobado aquello o sea no me enrede no me enrede porque no hay cuestión de tiempo en esto hubiera sido lo mismo

la semana próxima debatiremos este asunto a propuesta nuestra no lo trajo usted lo hemos traído nosotros los socialistas vascos hemos traído

sí señora llanos y debatiremos y aquí se retratará todos los grupos nos retrataremos

de una posición que fue de todas formas coherente en nuestro caso porque nosotros asimilábamos como creo que la que hizo de portavoz

que hizo en el consejo asimiló perfectamente la postura con la que habíamos mantenido en los presupuesto generales de la comunidad autónoma vasca de todas formas esto es un debate también se lo digo al señor urruzuno que lo veremos

sobre la convocatoria pública de empleo y

señor urruzuno cuando yo le decía que ustedes ya sé que

en la comisión de control de e i te be de que aparezca en la página web los sistemas de contratación

las personas designadas en e i te be

yo lo que sé lo que le estaba diciendo es que ustedes por lo menos en dos o tres ocasiones

de ir a lo directo que era por ejemplo cuando nosotros proponíamos

que se aplicase la misma normativa para la selección y para la gestión de las bolsas de trabajo que se aplicaba

la de las opes si nosotros decíamos que se haga lo mismo que cuando hay una ope en e i te be para las bolsas de trabajo y ustedes dijeron no se pusieron de acuerdo y muy legítimamente con los señores

presencia del consejo de administración en los procesos de selección en los procesos de asignación de puestos en las bolsas de empleo nosotros lo tenemos bien claro eso y además

votar a favor de eso dijeron un reglamento cuando llegue el reglamento ya hablaremos de él yo no sé si ustedes han preguntado a ver cómo está ese reglamento y lo de las licencias radiofónicas le digo a usted lo mismo

que se inste al gobierno a que inicie el proceso de adjudicación de las licencias radiofónicas y ustedes se pusieron de acuerdo con los señores del partido nacionalista para decir en dos meses habrá una respuesta llevamos once yo no sé si usted ha preguntado por cómo va eso yo sí he hecho alguna pregunta

yo no sé si usted ha hecho alguna no la he recibido entonces esto es lo que le digo por supuesto que tenemos que controlar al gobierno

y controlamos por nuestra parte por lo menos procuramos controlar y lo hacemos por lo menos

señora llanos comprendo sus dudas y nosotros también tenemos muchas dudas porque fíjese

que en la propia administración basándose en otros derechos

tome algún tipo de medidas preventivas a la hora de dar o hacer públicas algunas informaciones pues fíjese si eso

pura y dura qué no se va a aplicar a e i te be que funciona en un mercado digamos abierto y yo no sé si una empresa privada aunque sé que e i te be no es una empresa privada pero opera

para entendernos tiene que dar a conocer su política de precios por ejemplo que son decisiones o son sí decisiones estratégicas que no conviene hacer públicas en la medida en que la competencia puede lesionar tu cuota de mercado rentabilidad

tenemos muchas dudas y yo es ese al equilibrio al que apelaba y al que creo que

independientemente de eso insisto existen toda una serie de canales para conocer ese tipo de informaciones y yo tampoco voy a adelantar el debate de la semana que viene
yo creo que cada cosa a su tiempo y cada tiempo tiene su ambición eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna